egun on gracias señora presidenta señoras y señores parlamentarios lehendakari señora uriarte buenos días a todos bien como bien comité de seguimiento y asesoramiento tras las propuestas en relación con la capitalidad cultural europea españa designó a san sebastían

como ciudad capital cultural europea dos mil dieciséis como polonia

para el mismo cometido en ese mismo año son cuestiones que están ahí

de las capitalidades culturales lo recordaban recientemente y en ese sentido san sebastián representará a españa como

en el próximo año dos mil dieciséis recientemente hemos mantenido un debate a instancias de una proposición no de ley del grupo

cultural san sebastián dos mil dieciséis como recordábamos en ese debate y posteriormente en la interpelación que este parlamentario formulaba a la consejera

lo pretendido por este grupo es que españa tenga un feliz desarrollo

lo tenga en san sebastián dos mil dieciséis como tuvo una feliz andadura en la capitalidad green europea dos mil doce en la ciudad de vitoria gasteiz

que se responda a las consideraciones y al espíritu del proyecto original y que se busque y encuentre la suficiente financiación pública y privada son cuestiones importantes y en las que se deben de concentrar los órganos las estructuras la

de la fundación donostia san sebastián dos mil dieciséis el debate sobre todo y la resolución aprobada

incompleta y mi grupo a raíz de la interpelación planteada a la señora uriarte quiso aportar

el de la búsqueda de la financiación privada entre los cometidos que tienen que buscar quienes forman parte de la estructura organizativa fundacional de la

san sebastián dos mil dieciséis y desde luego el parlamento vasco y los grupos de este parlamento vasco esa instancia debía ser hecha

aprovechamiento de los apoyos de todo tipo en la financiación en la cobertura económica de ese acontecimiento

nosotros planteábamos entonces una moción clara y comprometida en la búsqueda de ese patrocinio en la búsqueda de ese apoyo económico

a esa capitalidad cultural a ese proyecto cultural español que nadie diga que no nos hemos y en este caso el gobierno vasco no se ha preocupado de ello sobre todo después de que además existen importantes condiciones para ello para esa búsqueda del patrocinio del mecenazgo

económico como todos ustedes saben el gobierno de españa a través de la prorrogación de la ley veintidós barra dos mil trece aprobó beneficios fiscales aplicables a san sebastián capital europea de la cultura dos mil dieciséis y ese es el camino que se trabaje también en la búsqueda de esos recursos y que con proyectos artísticos de relevancia y de amplitud se conecte se haga atractiva

se conecte con el mundo privado para precisamente obtener financiación recursos para esa iniciativa de excepcional interés como es donostia san sebastián dos mil dieciséis

presentamos nosotros después de la sustanciación de la interpelación del pasado pleno de control la moción siguiente

que decía lo siguiente el parlamento vasco insta al gobierno vasco

veintidós barra dos mil trece de presupuestos generales del estado para dos mil catorce y a la vista de lo establecido

beneficios fiscales aplicables a donostia san sebastián capital

contactos y actuaciones para conseguir patrocinio y apoyo económico de empresas y sectores de la iniciativa privada a ese considerado acontecimiento de excepcional interés como lo valoraba esa ley de presupuestos generales del estado hablábamos también en esa moción inicial que

encuentros entre empresas y otros agentes de la iniciativa privada y las instituciones implicadas para conseguir financiación privada para las propuestas de la capitalidad europea de la cultura también de una manera lógica y normal instábamos a la consejera

sobre el desarrollo y avance de las propuestas y proyectos culturales de san sebastián

esa propuesta de moción ha tenido un efecto inmediato

en la transacción que el partido nacionalista vasco el partido socialista han firmado con bildu se ha incluido la consecución el trabajo por conseguir apoyo económico de empresas y sectores de la iniciativa privada

original la transacción definitiva me parece que

el aspecto que nosotros pretendíamos en nuestra moción original nosotros con esta actuación podremos sin injerencias desde luego seguir

que nos informe sobre los pasos que se han dado para esa participación privada para ese apoyo privado de empresas de iniciativa privada en el proyecto cultural

injerencias será preocupación porque las cosas se hagan bien en cualquier caso eso tan importante que es el proyecto de san sebastián donostia dos mil dieciséis

y bildu nosotros como he dicho antes el punto número cuatro el que dice que el parlamento vasco insta al gobierno vasco como miembro del patronato y a tenor de las recomendaciones realizadas desde bruselas a que vele por el buen cumplimiento de las

económico de empresas y sectores de la iniciativa privada a este considerado acontecimiento de excepcional interés

que había quedado pendiente en el debate anterior en la iniciativa anterior se concretara de alguna manera sobre todo a la vista de lo que ya he recordado antes a la vista de las condiciones también importantes también extraordinarias que la ley veintidós barra dos mil trece de presupuestos generales del estado para el dos mil catorce da los beneficios fiscales aplicables a donostia san sebastián

en relación con esta cuestión eso es importante el resto de las cuestiones forman parte de lo ya dicho seguramente

el planteamiento recogido que nosotros hacíamos en la moción

señora presidenta lehendakari consejeras señorías buenos días los socialistas presentamos ante esta iniciativa una enmienda

el tema de la capitalidad cultural europea san sebastián dos mil dieciséis siempre con un espíritu constructivo porque lo que pretendemos es en definitiva es que este tema acabe en una organización exitosa

y con nuestra enmienda pretendíamos tres objetivos que creemos que en cierto modo se han logrado a través de la enmienda transaccional no es una enmienda que mejora el texto de la enmienda socialista pero sí es una enmienda que ha intentado buscar

a través de una enmienda transaccional se consigue mejorar o completar un texto no tiene por qué y en este caso yo creo que no lo mejora pero sí

logramos tres objetivos que a nuestro modo de ver son importantes por un lado la visibilidad del compromiso del gobierno vasco con la capitalidad europea de la cultura san sebastián dos mil dieciséis

en aquellas acciones del gobierno tanto de comunicación de publicidad o marketing

en cualquier foro institucional económico o cultural que se considere oportuno de la defensa de este proyecto cultural estratégico para la ciudad para el territorio para el país entendemos

que mantener pero sí nos parece relevante el hecho de que el gobierno vasco se comprometa a defender en esos foros institucionales económicos y culturales este proyecto que es estratégico

dos semanas que al gobierno vasco le correspondía promocionar y socializar el proyecto

cultural excepcional resulta muy evidente que la visibilidad del compromiso institucional con este proyecto que es excepcional que es prioritario y que es estratégico se hace más que necesaria incluso imprescindible como segundo objetivo de nuestra enmienda era que el gobierno vasco

por el cumplimiento en las recomendaciones del comité de seguimiento y asesoría

se ciña al espíritu del proyecto inicial y se concrete con acciones determinadas se nos ha dicho que en el mes de marzo el equipo técnico presentará ese programa cultural

y su rol respecto a la capitalidad europea una labor de conducción de ayuda y de supervisión que no implica

políticamente en el proyecto pero sí sí que debe supervisar conducir y velar porque realmente el proyecto se ajuste a lo que era

inicial con el que se hizo la solicitud de la capitalidad el tercer objetivo de nuestra enmienda era el de instar a todos los patronos a todos los miembros del comité ejecutivo de la fundación a que activasen

patrocinio y apoyo económico desde la iniciativa privada aprovechando en este caso como otros elementos los beneficios fiscales que se establecían

de todos los patronos de la fundación es entendible que algunas instituciones crean que el liderazgo de esta labor de búsqueda de financiación privada le corresponde al ayuntamiento de san sebastián y al alcalde a su cabeza que es el que debiera estar removiendo cielo y tierra para buscar patrocinios espónsores

privada en definitiva promover alianzas de colaboración diversa buscar la proyección internacional de la ciudad etcétera pero como eso no está ocurriendo y me temo que no va a ocurrir los socialistas entendemos que se precisa por parte de las instituciones un compromiso de compartir contactos

y ponerlos a disposición de la capitalidad dos mil dieciséis en un aprovechamiento máximo de las sinergias institucionales

esto se prolonga hasta el año dos mil veinte y un criterio básico para las ciudades candidatas era

la solidez del apoyo institucional un apoyo institucional sólido que permita proyectar san sebastián dos mil dieciséis como el resultado de un proceso de participación abierto

un apoyo institucional sólido es imprescindible porque la capitalidad europea de la cultura donostia san sebastián dos mil dieciséis y no son frases mías es la oportunidad que esperábamos

e impulsarla internacionalmente con nuevos proyectos e innovar la vida cultural porque la imagen de una ciudad que se conforma con lo que tiene es una imagen aterradora porque esta es una oportunidad incomparable para dar el salto de la autocomplacencia a la confianza en nosotros mismos

crítico y sensato san sebastián debe erigirse

de otra manera de entender la cultura y sus celebraciones la capitalidad cultural

y a largo plazo que requiere por tanto de implicación y complicidad

de las instituciones y por eso pedimos al gobierno vasco que actúe con responsabilidad que se implique en este proyecto haciéndolo suyo creyéndoselo

socializar este proyecto de capitalidad y volver a generar ilusión en la ciudadanía si el gobierno vasco y las demás instituciones solo están en este proyecto por cumplir

yo espero y animo al gobierno vasco a que actúe en el ámbito de sus responsabilidades para con la capitalidad europea de la cultura san sebastián dos mil dieciséis proyecto prioritario y estratégico propio de iniciativa propia se tratara que lo mime que lo apoye que lo impulse y que también sea exigente

y desarrollo para cumplir entre todos y con todos los objetivos de esta oportunidad que vuelvo a repetir es única muchas gracias eskerrik asko corcuera

zurea da hitza sí muchas gracias me ha convencido la portavoz del grupo nacionalistas vascos votaré a favor de la transaccional

la anterior declaración que en transacción firmó el grupo nacionalista con bildu de completar alguna de las cuestiones que quedaban pendientes y en ese sentido

se insta como nosotros pretendíamos al gobierno vasco efectivamente se suaviza un poco la posición se insta al gobierno vasco como miembro del patronato a que vele por el buen cumplimiento en relación con lo que hemos hablado antes apoyo económico patrocinio de sectores de la iniciativa privada en relación con esta cuestión

dos mil dieciséis pero así es decir esta instancia de velar

con capacidad para pedirle explicaciones para pedir qué pasos se están dando en el seno de ese órgano donde el gobierno vasco también participa y donde el gobierno vasco también tiene que tener una actitud proactiva dinámica en relación con esa búsqueda y yo supongo que no me cabe ninguna duda que a la hora

una actitud protagonista no solamente contemplativa o no solamente de testigo sino protagonista

con esas cuestiones todo lo demás el objetivo

con esa cuestión como ya se ha planteado todo lo demás forma parte de lo normal es decir que el parlamento vasco manifieste su apoyo a donostia san sebastián para que desarrolle su andadura

queremos que eso ocurra que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a hacer visible su compromiso de capitalidad

institucionales económicos culturales oportunos ese proyecto estratégico es una buena aportación que faltaba también para que se implique también y desde luego porque

y eso es lo que españa ha considerado que san sebastián dos mil dieciséis es bueno

el país vasco para gipuzkoa para san sebastián y para todos y en ese sentido hacer visible ese compromiso que es un compromiso que entronca esa realidad con la europea está bien claro que

el comité de asesoramiento y seguimiento de las capitalidades culturales y que el parlamento vasco reclame que el equipo técnico de la fundación donostia san sebastián pueda llevar a cabo su actividad sin ninguna injerencia

del comité de seguimiento y asesoramiento de las capitalidades culturales

hoy en este pleno como lo que hicimos el otro día no es ninguna injerencia política y las preguntas que le podamos hacer o las solicitudes de comparecencia que podamos hacerle a la señora uriarte no van a ser ninguna injerencia van a ser van a ser preocuparnos por el proyecto que salga bien

y muchas preocupaciones en relación con el papel fundamentalmente del

nosotros se lo manifestamos al gobierno vasco para que vele verdaderamente porque ese sea un proyecto exitoso y porque

de las amenazas que se reflejaban en el informe del comité de asesoramiento y seguimiento en relación con los riesgos que puede tener ese proyecto si no se cumplen algunas de sus consideraciones y por eso mismo hemos instado

tribuna que los socialistas vascos estamos convencidos de que este proyecto estratégico

de liderazgo de apoyo y de socialización del proyecto de la capitalidad para nosotros eran claves tres asuntos por un lado la financiación del proyecto

efectivamente no le corresponde a él hacer esos contactos pero sí poner encima de la mesa los espónsores los patrocinadores con los que habitualmente en su actividad

todos los patronos de la fundación donostia dos mil dieciséis porque solamente así se conseguirá realmente un empuje y un impulso para que la iniciativa privada se implique

el sesenta y tres por ciento de la financiación asegurada y que sea una financiación pública toda ella por cierto que también ya es hora de que el gobierno de españa

a este proyecto porque a día de hoy no están puestos y una función de colaboración y no de ingerencia política es la que ha tenido lugar cuando los presupuestos generales del estado para el año dos mil catorce el gobierno del señor rajoy había planteado

de aportación a la capitalidad y fueron los grupos municipales del ayuntamiento de san sebastián el grupo municipal socialista quien hizo la denuncia

para un proyecto de esta envergadura y también el portavoz del grupo municipal popular del ayuntamiento de san sebastián fue quien hizo las presiones suficientes

haber si entre todos empujamos y llegamos a los once millónes quedan tan solo

que por eso es importante cómo encajar la colaboración de los patronos en la financiación privada y es posible no se puede dejar todo esto en manos de una agencia externa esperando a ver qué pasa o qué dicen va a hacer falta mucho esfuerzo mucho trabajo mucho tesón para conseguir culminar con éxito este proyecto un proyecto que de verdad los socialistas que hemos impulsado porque hemos apostado y apostamos porque la cultura y la educación en valores sean instrumentos de cambio y de transformación social porque son instrumentos imprescindibles para hacer frente al reto actual

y de todos en definitiva el aprender a vivir juntos gentes diferentes hay una idea fuerza en todo este proyecto que tiene que actuar como estímulo y como acicate y es que

la cultura de lo que ya somos lo que ya tenemos o lo que vendrá como si se tratara de un gran escaparate queremos apoyarnos en la cultura para cambiar y solamente ese cambio será el que permita afrontar el futuro como ciudad como territorio y como país con mejores expectativas que las actuales

del tema de la no ingerencia política no sé que tipo de bandera en este proyecto la no ingerencia política no significa

vale para el equipo técnico de la fundación donostia dos mil dieciséis ese equipo técnico presentara su programa a finales de marzo pero es labor de los patronos supervisar ese proyecto conducirlo decir que no está bien criticarlo y luego cuando llega el consenso apoyarlo al máximo

todo vale en este proyecto todo no vale todo no vale y hay que estar muy encima

muy poco tiempo muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señores consejeros señoras consejeras señor lehendakari precisamente

mañana veintiocho de febrero hace un año que se trajo este asunto al parlamento vasco

subordinadas emitidas por fagor y eroski y comercializadas por diversas entidades

consecuencia de lo cual miles y miles de ciudadanos vascos se sintieron claramente perjudicados y en todo caso muchos de ellos se sintieron claramente

por esta injusticia evidente que nosotros percibimos que decidimos traer este asunto a este parlamento por primera vez ya digo hace mañana justo un año ya dijimos entonces que no pararíamos hasta que pudiera hacerse justicia que nosotros

y que teniendo en cuenta nuestras fuerzas íbamos a tratar de defender con ahínco

de los afectados los intereses de miles de ciudadanos que han sido estafados y

hemos debatido mucho en relación a esta cuestión ha habido comparecencias ha habido interpelaciones ha habido preguntas ha habido mociones

la última veremos si es finalmente la última o si más adelante puedan surgir

que puedan tener ese mismo objetivo de tratar de localizar a los responsables de lo que nosotros consideramos un evidente fraude

al consejero donde le preguntábamos sobre los objetivos del gobierno sobre la idea que tenía el gobierno para hacer cumplir

del día seis de junio del año pasado nosotros pensamos que ese acuerdo parlamentario y creo que así lo piensa una mayoría de los grupos el gobierno vasco no lo ha cumplido y de ahí que pudiéramos presentar finalmente

por parte de upyd con el añadido de dos puntos referidos a la fiscalía general del estado y a la intervención general del estado en todo caso nosotros lo que proponíamos en esta moción es volver a instar al gobierno vasco a defender el interés

estableciendo un servicio de atención a los afectados desde donde se les facilite toda la información y todos los medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos y articulando si fuera necesario un canal de ayudas para hacer frente a las actuaciones judiciales que los afectados pudieran a cabo esto es básicamente lo que se aprobó el pasado día seis de junio en nuestra opinión y así se lo dijimos al gobierno no cumplió este mandato

hemos querido añadir dos puntos proponemos que este parlamento inste a la fiscalía general del estado a que inicie diligencias de investigación

y la comercialización por parte de distintas entidades financieras de las aportaciones financieras subordinadas consecuencia de lo cual miles

perjudicados y proponemos también instar a la intervención general del estado a elaborar un informe que incluya un análisis relativo

en el control y la inspección de la emisión y comercialización de estas aportaciones financieras subordinadas

se aprobó el pasado día seis de junio una transaccional con varios puntos lo cierto es que durante todos estos meses desde el pasado día veintiocho de febrero el gobierno vasco el propio consejero la directora de kontsumobide han venido reiterando en sus distintas comparecencias

han venido reiterando que ellos digamos que no han hecho otra cosa más que cumplir lo acordado por este parlamento y en concreto se refería a la transaccional acordada entre el partido nacionalista vasco y eh bildu del veintiocho de febrero del año pasado y es cierto que en aquella iniciativa

pero desde entonces también se han pedido otras cosas y en concreto también se aprobó esta transaccional y en concreto también se aprobó el punto

número cuatro de esa transaccional

sigue sin cumplirse y que nosotros queremos reiterar con esta iniciativa por su parte el grupo socialista hace referencia al acuerdo alcanzado a la propuesta que eroski de acuerdo con las entidades financieras comercializadoras alcanzó

alcanzó con las distintas entidades financieras en relación a este asunto en concreto la quita del treinta por ciento del valor nominal entrega de un quince por ciento en metálico

por obligaciones a doce años y a partir de ahí el grupo socialista lo que proponía y lo que propone en su iniciativa original que se ha acumulado con la nuestra

subordinadas lo cierto es que la comisión nacional del mercado de valores mucha confianza a nosotros no nos da porque

circunstancias ni cumplir con sus obligaciones en el caso tanto de la emisión de las preferentes como de la emisión de las aportaciones financieras

upyd presentó la correspondiente querella

y autorizada por la comisión nacional del mercado de valores en todo caso es lo que proponía el grupo socialista encomendar a la comisión nacional del mercado de valores esa labor en su punto número dos lo que básicamente propone el grupo socialista es

el acuerdo alcanzado mejorar el canje alcanzado y finalmente pretende y propone instar al gobierno vasco a defender

no lo ha hecho se trata por lo tanto de que el gobierno defienda con ahínco con decisión con todos los medios claramente los intereses de los afectados y en nuestra opinión

en absoluto hay alguna otra enmienda presentada por algunos otros grupos entre ellas la planteada por el grupo nacionalistas vascos en la que

entre la emisora eroski y los diferentes bancos comercializadores nos parece evidentemente que se queda muy corta nosotros

sino que defienda los intereses y los derechos de los ciudadanos

hemos dicho que nos parece claramente injusto y a partir de ahí y acumulando tanto las propuestas del grupo socialista como las propuestas de upyd hemos llegado a esta transaccional que se someterá a votación

la emisión y comercialización de las aportaciones financierassubordinadas de eroski y fagor

las entidades emisoras volver a exigir al gobierno vasco a que defienda el interés de los afectados de euskadi por las preferentes y por las aportaciones financieras

instar también a la fiscalía general del estado y a la propia fiscalía del país vasco a que actúen de oficio para investigar las situaciones abusivas que se han producido y mostrar también nuestro rechazo a la actuación de la directora de kontsumobide y del consejero de salud y consumo en relación

dijo que los afectados básicamente tienen tres posibilidades que es aceptar el canje quedarse como están y optar por la vía judicial bien a través de demandas individuales o bien a través de demandas colectivas lo cierto es que la señora unzueta no dio toda la información

supondría gastos en abogados gastos en procurador gastos en tasas y otros gastos y planteó la idea de que esto supondría

pero lo cierto es que la señora unzueta la directora de kontsumobide no precisó como elaboró estas cuentas ni tampoco matizó que en muchas sentencias

que en todos los casos conocidos ha sido la banca comercializadora y aunque es cierto que estas resoluciones obligan al ahorrador a reintegrar los intereses cobrados

con el interés legal del dinero es decir que la señora unzueta no dio toda la información que requería no dio toda la información que tenía y que ella conocía que también se incluye ese punto número cinco en la transaccional que finalmente hemos firmado en el punto número seis instamos al gobierno

de los consumidores cosa que hasta ahora no ha hecho y finalmente en el punto número siete recogemos el punto cuatro de aquella iniciativa del seis de junio que no se ha cumplido es decir instamos al gobierno vasco a establecer un servicio específico de atención a las personas afectadas

toda la información y todos los medios necesarios para poder ejercer cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos articulando

a dichas actuaciones judiciales este punto en concreto ya se aprobó

el gobierno sigue sin cumplirlo y de ahí que lo hayamos incluido en esta transaccional en fin esperamos que este

cuente con el apoyo favorable de otros grupos en concreto me refiero también al grupo popular que no ha presentado enmienda creo que

para llegar a una solución justa para que se haga justicia para que se localicen a los responsables y los

sus ahorros esto es al menos lo que pretendemos dijimos en la última comparecencia del consejero y de la propia directora de kontsumobide que el partido no había acabado y efectivamente nosotros consideramos que el partido no ha acabado

en relación a la deuda perpetua de la cooperativa de consumo daba por finalizada esa labor de mediación nosotros no damos por finalizados los trabajos que creo que debemos llevar a cabo para como digo pueda hacerse justicia

último es defender los intereses de miles de ciudadanos estafados este es el propósito con el que se firma esta transaccional por esto

al resto de grupos a todos los grupos que crean en la justicia pedimos el voto por lo tanto para todos los grupos de la cámara para que pueda salir adelante esta transaccional

cuyos ahorros están atrapados en las aportaciones financieras subordinadas de eroski y de fagor

que siguen esperando una solución digna a su problema es un problema que les afecta directamente

a su sentir diario a ellos y a sus familias por eso queremos hablar hoy los socialistas de esta situación que están viviendo son ahorradores

la defensa de las instituciones y más concretamente del gobierno vasco sí señorías de esto queremos hablar y de eso es lo que llevamos haciendo desde hace

solicitudes de información interpelaciones mociones proposiciones no de ley más de veinticinco iniciativas

sobre este asunto y el entonces acuerdo alcanzado y suscrito por los nacionalistas vasco y por el grupo euskal herria bildu

llevando a las personas afectadas a una situación de indefensión y desamparo del actual gobierno vasco

es la opinión mayoritaria de aquellas personas que están esperando a que este gobierno les mire les vea les escuche y sobre todo lo más importante les defienda los socialistas vascos entendemos que se hace necesario fijar una posición desde este parlamento

de forma adecuada a los ciudadanos que han visto y están viendo lesionados sus derechos como consumidores necesitamos una propuesta de actuaciones

una vez más reconducir esta situación es lo que nos han pedido las personas afectadas que desde este parlamento demos una salida digna a su problema que hagamos valer sus derechos

y que denunciemos la inaceptable actuación de kontsumobide y cuando me refiero a kontsumobide me refiere a quien dirige

este instituto con el aval del gobierno nacionalista

por los socialistas vascos y upyd y que a día de hoy

consciente porque este gobierno ha renunciado desde sus inicios a la defensa de los derechos de las personas con nombres y apellidos afectadas por

hoy debatimos de nuevo dos propuestas una moción consecuencia de interpelación que metió hace quince días el grupo upyd y una proposición no de ley que presentó hace un mes el partido socialista upyd

en esta materia algo sobre lo que no tenemos ninguna objeción que hacer al contrario que el ministerio público vele por los derechos que se han vulnerado

muy oportuno pero no queremos que se desvíe el foco los socialistas consideramos muy importante someter a la consideración de esta cámara una posición

no era nuestra intención inicial pero hemos asistido al lamentable espectáculo de un gobierno que está incumpliendo lo previsto en la ley

y su propio código ético un gobierno que está haciendo dejación sobre la defensa de los derechos de los afectados

como es la judicial y omitido información vamos primero a hablar de la ley de creación de kontsumobide y leo

debe colaborar activa y económicamente en el asesoramiento defensa e información de los consumidores

e impulsar protección legal efectiva de las personas consumidoras y usuarias iniciando las acciones judiciales pertinentes y personándose en las que se refieren

que hay que proteger o de la alarma social que generan esto lo recoge la ley fundacional de kontsumobide en su artículo cuatro según nos dijo hace unos días la directora de kontsumobide

por el consejero hoy aquí presente el señor darpón no solo

ni siquiera sancionadora así lo hizo

con un gobierno socialista sí entonces sí se sancionó a una entidad bancaria por incurrir en cláusulas abusivas hecho que lo avaló posteriormente en los tribunales me parece importante resaltar que la señora unzueta el pasado diecisiete de febrero

interés en advertir que defender los derechos de los ahorradores por la vía judicial es más costoso económicamente que aceptar una propuesta de canje indecente

este gobierno que es mejor no acudir a los tribunales siempre que se acude a los tribunales a defender un derecho hay que afrontar las lamentables tasas que impuso el señor rajoy

ya lo sabemos qué hace el gobierno vasco ante esto en qué utiliza el fondo de asistencia jurídica con el que cuenta que hay que pagar abogados y procuradores ya los sabemos sí claro pero el gobierno nacionalista obvia decir que hasta ahora los tribunales han dado la razón a los demandantes y que las costas

en las sentencias a la parte fuerte del caso que son hasta el momento las entidades bancarias por qué kontsumobide en la carta que dirige a los afectados informando de las posibilidades del canje oculta las posibilidades del recurso a la justicia

estos afectados puedan decidir qué prefieren por qué no se cuenta que quien no acepte el canje y quiera recuperar todo lo invertido si la justicia le da la razón como hasta ahora puede volver a invertir ese dinero en productos seguros y con la rentabilidad media del mercado

subordinados de un nuevo producto sin garantías de recuperación ni siquiera dentro de doce años por qué kontsumobide no menciona la quita del treinta por ciento en la carta que envía a los afectados que hicieron la reclamación a través del instituto quién le ha dicho al gobierno que diga que lo mejor es el canje nosotros

pero lo que hace el gobierno nos fuerza a pedir que se fije su posición en este parlamento sobre el canje porque hay afectados que quieren saber

es nuestra obligación hacerlas ver ya que kontsumobide no lo está haciendo

cinco punto dos punto tres referido a transparencia y gobierno abierto

de forma fidedigna y completa información a la ciudadanía sobre los procedimientos informes estudios y razones de sus decisiones así como especialmente

la transparencia vendrá acompañada de una apuesta decidida y cada vez más exigente por el gobierno abierto y en especial de un compromiso de informar detalladamente sobre todas aquellas decisiones o actos que tengan implicaciones financieras su guía de actuación será salvaguardar la estabilidad presupuestaria y el endeudamiento sostenible y kontsumobide

de la ley también ha incumplido este precepto sí señorías así es no lo digo yo

falta de rigor falta de transparencia falta de información y falta de ética todo eso acumula el instituto

y el consejero que lo avala y el gobierno que lo sujeta ante esta dejación de responsabilidad en la defensa de los consumidores por parte del gobierno insistimos

en la propuesta que hemos presentado y que luego hemos transado e incorporado a las aportaciones que hacía la moción de upyd es cierto

para que audite de oficio la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas emitidas por cooperativas y comercializadas por entidades bancarias para comprobar si se ha cumplido con las exigencias establecidas de protección a los clientes de productos híbridos

de comercialización fraudulenta la comisión nacional del mercado valores deberá instar a la entidad bancaria que los ha comercializado

en segundo lugar decía la propuesta socialista que el parlamento vasco insta al gobierno de españa a que regule las operaciones de canje que puedan ofrecer las entidades emisoras no décimos que se mejore la que hay señor maneiro décimos que un canje

al nominal de la inversión y como una de las alternativas debe siempre figurar el canje por bonos no subordinados ahí está la clave no subordinados sin subordinación y en un plazo no superior a cinco años eso es lo que plantea el grupo socialista

de todas las competencias a su alcance y recordemos

defienda el interés de los afectados de euskadi por las preferentes y las aportaciones financieras subordinadas y haga valer estos intereses ante la comisión

y ante el gobierno de españa y mantenga esa defensa en el caso de quienes decidan acudir a los tribunales no entendemos que la propuesta tenga que ser avalada porque esta desde luego no es

para las personas afectadas el parlamento vasco en cuarto lugar recoge la propuesta socialista insta a la fiscalía general del estado y a la fiscalía del país vasco a que actúe de oficio para investigar denuncias de situaciones abusivas en la comercialización de productos financieros en quinto lugar el parlamento vasco este punto para nosotros es muy importante muestra su rechazo a la actuación de la directora de kontsumobide

por desalentar a los ciudadanos en el ejercicio de la defensa de sus derechos en todos los ámbitos que incluye la vía judicial al ofrecerle solo datos parciales para poder tomar una decisión en este sentido pide a la comisión que vela por el cumplimiento del código de ética y buena conducta

sobre todas las posibilidades en la defensa de sus derechos y la manipulación de los datos sobre los costes del recurso a la justicia puede ser sometido a actuación por parte de dicha comisión

insta a kontsumobide que en aplicación de la ley por la que se crea el instituto vasco de consumo

y vele por la protección legal efectiva de las personas consumidores y usuarias iniciando las acciones judiciales pertinentes y personándose en las que se refieren a asuntos que merecen especial atención por razón de la trascendencia de los derechos que hay que proteger

en definitiva la ley fundacional de kontsumobide hemos una transaccional con el grupo upyd que entiendo se someterá a votación del resto de los grupos yo he visto las enmiendas que había presentado euskal herria bildu y el grupo nacionalista el grupo nacionalista ha retirado

no me extraña porque desde luego que nosotros en ningún momento entendíamos porqué habían metido ese texto y euskal herria bildu tiene tres puntos en el que insta al gobierno vasco a no admitir entre las soluciones que se plantean

y a cumplir la moción del seis de junio que es lo que estamos recogiendo en nuestra transaccional

en la que las aportaciones subordinadas no tendrán cabida como sistema financiero de cooperativas

eh bildu porque esa propuesta ya vino aquí de manos del grupo socialista se presentó la modificación de la ley de cooperativas para eliminar el artículo cincuenta y siete punto cinco y ustedes

euskal herria bildu no va a apoyar las iniciativas que aquí se han presentado por parte del partido socialista de euskadi y upyd ni su enmienda de transacción

ya que creemos que no solo es la que realmente va a dirigir a conseguir que este problema pase a un nivel verdaderamente resolutivo sino que creemos que es la única que acercaría el final del problema para los y las afectadas sin juegos malabares

no se puede aceptar que un gobierno avale políticamente como solución al problema de las aportaciones subordinadas más aportaciones subordinadas

debemos decir claramente a la ciudadanía que el canje que se ha puesto sobre la mesa es un producto financiero de muy alto riesgo de ahí esos intereses si no no existirían no se puede admitir ni poner en circulación un producto de alto riesgo y esta vez con el consentimiento explícito de un gobierno

no publiciten ustedes que es una buena solución porque no lo es no digan públicamente que esta vía es mejor que las demás no den datos que nos son ciertos

el gobierno vasco debe dar una solución a los problemas de los y las afectadas y no crearles más los y las afectadas quieren sus ahorros

laguntzeko kanala pedimos el cumplimiento de la moción aprobada el día seis de junio esa moción era absolutamente clara en todos y cada uno de sus puntos

dicha moción el gobierno vasco debe respetar de una vez a esta cámara y a los y las afectadas el texto de dicha moción lo decía claro

por no defender y proteger a las personas consumidoras y a sus intereses si este gobierno avala públicamente y no se desmarca de la conveniencia de que los y las afectas acepten la oferta de canje tendremos que pedir otra reprobación

no de la directora de kontsumobide esta vez será la del propio consejero de salud y consumo continuo leyendo el texto de aquella moción

y en concreto expresa su repudio por todas las prácticas económicas y financieras desplegadas para realizarlas basadas en conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables incluida la comercialización engañosa y fraudulenta de determinados productos financieros

de esto mismo estamos hablando con el canje se intenta conseguir la confianza de la ciudadanía para en este caso darles otros productos subordinados y cómo se hace pues bien sencillo ofreciendo altos intereses exactamente lo mismo que se hizo en su momento cuando las entidades comercializadoras

el gobierno vasco no puede por ello avalar políticamente este canje repito de nuevo no puede colaborar con aquellas entidades financieras que engañaron a los y las pequeñas ahorradoras y las estafaron retorno a la citada iniciativa en su tercer punto que decía lo siguiente

insta a las entidades emisoras y a las entidades bancarias colocadoras a que adopten las medidas necesarias para que se proceda a rembolsar de forma inmediata el cien por ciento del capital invertido

y sin formación suficiente que así lo deseen y a todos aquellos consumidores a quienes se les trasladó una información insuficiente tendenciosa incompleta o engañosa

a que se reúnan con los y las afectadas para encontrar una vía de solución euskal herria bildu en la comisión en la que participó el consejero y la directora de kontsumobide

se nos hizo saber que no todas las entidades financieras estaban dispuestas a negociar tenemos derecho a saber cuáles la sociedad tiene derecho a saber cuáles son esas entidades financieras que después de estafar a la ciudadanía van a salir inmaculadas de esta estafa financiera un gobierno debe estar con la ciudadanía y defender sus intereses y no los intereses de la banca se llame banco santander

y el ultimo punto de aquella moción el cuarto el parlamento vasco insta al gobierno vasco al establecimiento de un servicio de atención a los y las afectadas por las participaciones preferentes o subordinadas o productos financieros o bursátiles similares de entidades financieras y empresas

cuantas actuaciones judiciales sean precisas en demanda de sus derechos y si fuera necesario se articule un canal de ayudas para hacer frente a dichas actuaciones judiciales

para que las ayudas lleguen a tiempo y por ello y viendo la actualidad creemos que el plazo de un mes sería necesario vuelvo a la enmienda que hemos presentado hoy nuestro tercer punto es el siguiente

el día seis de junio aunque la señora

el gobierno debe traer la nueva ley de cooperativas y en dicha ley

para ello se debe abrir un diálogo multiparte entre todos los afectados por esa modificación es decir cooperativas entidades financieras gobierno vasco y parlamento vasco nos gustaría también contar con la responsabilidad del gobierno para hacer que esto que le pedimos desde euskal herria bildu

tomado en consideración y planteado así en su propuesta de ley por concluir

que lo debería haber hecho mucho antes o si la cnmv debe auditar o no ya que sería poner a mario conde a auditar a blesa

sabemos quiénes son los culpables lo hemos tenido claro desde el inicio son las entidades comercializadoras y así lo están diciendo los jueces

ninguna propuesta de las que se presentan aquí mejora lo que fue aprobado el seis de junio ni aporta soluciones para los y las afectadas salvo la que proponemos desde euskal herria bildu así que pongámonos a dar soluciones que estamos en el camino acertado y dejemos

y alejar la solución al problema mucho trabajo nos queda

muchas gracias señora presidenta cuando vino este debate y este asunto por primera vez a esta cámara

y que los que quisieran jugar con este tema estaban en su derecho de hacerlo pero yo ahí tengo que sorprenderme

ocho puntos en ninguno de los puntos se habla ni de fagor ni de eroski no aparecen ni citados veo la enmienda de bildu y tampoco aparecen citados y veo la que en su momento hizo el partido nacionalista vasco y tampoco aparecen citados señor maneiro nos dice que esto que han presentado ustedes es para intentar localizar a los responsables

las aportaciones financieras subordinadas a ver quién las ha emitido los bancos no fagor

fagor no estaba como está ahora y por lo tanto todo lo que se diga aquí hoy pues a fagor ya no le afecta porque eso está en el juzgado

por lo tanto vamos a ver si nos centramos todos en lo que

de las aportaciones subordinadas de eroski que al parecer es de muy alto riesgo para bildu porque supongo que confía poco y para otros grupos confía poco en la solvencia de dicha empresa por eso es de tan alto riesgo y se ha calificado así nos dicen ustedes que rechazan el acuerdo que se ha pero oiga pero no sé ustedes tienen participaciones o aportaciones subordinadas

cuando no sé si se han dado cuenta de lo que están hablando pero en fin cuando alguien compra un producto financiero y no está

en cómo le ha ido o cómo le puede ir tiene muchas opciones todas individuales si alguien le ofrece un acuerdo un canje lo podrá aceptar o no nadie está obligado nadie está obligado

pero lo que el señor maneiro o al partido socialista o a upyd o yo que sé o a mí nos parezca es indiferente

porque nadie de los que estamos aquí les podemos decir ni que acepten ni que no acepten ni que acepten ni que no acepten

y yo creo recordar y voy a recordarlo otra vez que a mí nadie me va a convencer

aportaciones financieras que los señores cooperativistas que son los que acordaron en sus consejos de las cooperativas de emitirlas en esas condiciones ahora son los perjudicados y lo dije hace más de un año y lo vuelvo a decir aquí ahora

sabemos quién es el culpable pues claro el que tiene el dinero de los ciudadanos quién lo tiene claro quién lo tiene los bancos no

de las aportaciones subordinadas de eroski eroski

vamos a ver o de qué se trata aquí se trata de decir que como los bancos son muy malos y los bancos tienen que pagar aquí

pues ya le digo yo que antes o después los jueces le van a decir que eso no es así que existe un término jurídico que es que esto del enriquecimiento injusto de algunos es incompatible con la ley y por lo tanto al final el que tiene el dinero

yo lo que no puedo entender es porque todos ustedes que están tan afectados y defienden tanto

en ninguno de los párrafos le dicen a eroski que devuelva el dinero

no lo entiendo no lo entiendo si es una estafa como se ha dicho aquí por determinados portavoces que han salido

es que al estafador que tiene el dinero

y como nosotros dijimos desde el principio no nos parece una estafa

es muy posible que algunas personas que han invertido en ese producto no supieran exactamente cómo funcionaba ese producto y que por lo tanto esas personas no todas esas personas tienen derecho a acudir a los tribunales y evidentemente a que kontsumobide con sus competencias

será que es que a ninguno de los afectados les corresponde la justicia gratuita claro

tan humilde que para acudir a un juzgado sí sí señor maneiro sí sí que para acudir a un juzgado a defender sus derechos no le corresponde la justicia gratuita

para que no le corresponda porque si tiene derecho ni hay tasas ni hay pago de abogado

si de verdad a alguno de ustedes les interesa el asunto y defender los derechos de los ciudadanos pues explíquenlos bien ya que se quejan de cómo kontsumobide los ha explicado tan mal ustedes explíquenlo bien

y entonces ahora resulta que la comisión nacional de valores tiene que decir y yo le tengo que recordar a la señora sarasua

y que en la comisión nacional del mercado de valores que dio el visto bueno a todo esto había unos señores que eran socialistas entonces que nos venga ahora el partido socialista

que actuó mal que dio el visto bueno a esas aportaciones y los dio mal incluso como alguien ha dicho vamos no se podía esperar nada menos que de esa gente que había ahí y usted está

basta con que vaya cualquiera de los están ustedes aquí si es que les preocupa tanto lo de instar a las fiscalías a la del país vasco a la del estado a todas

pero a qué viene instarle a la cnmv o al gobierno no eso ya pasó

cuando lo examinó y dio el visto bueno y le pareció que era correcto

a qué viene por qué nadie habla es que esto es fantástico

que si no supiéramos de qué estamos hablando dentro de cinco años nadie sabe estas aportaciones subordinadas quién las había emitido qué pasó con esto hablamos en etéreo

yo creo que lo dije en su día que flaco favor estaban haciendo algunas empresas

por jugar algunos con este tema la desgracia es que una de ellas ya está como está y por lo tanto da absolutamente igual porque van a ser los jueces los que decidan cómo va a terminar luego hay otra cosa que no termino de entender del partido socialista

nos dice usted que lo que más le molesta del canje que se ha propuesto

subordinadas significa que en caso de quiebra son los últimos preferentes de acreedores a la hora de cobrar eso es lo que significa

que se opone al canje propuesto porque dan unos intereses muy altos y eso es oiga pero es que lo que no es defendible

que compra un producto financiera que le da un siete por ciento y mientras lo está cobrando que por cierto siguen sobrando todos ellos esos intereses a día de hoy porque no ha dejado de cobrarlos nadie lo que no es

hay que prohibir que una empresa por ejemplo porque no es el banco el que engaña a la gente diciendo que el tipo de interés es el del siete por ciento el banco no paga el siete por ciento

en este caso paga eroski ese tipo de interés debiera usted de saberlo

en esta propuesta de canje diciendo les vamos a dar el seis o el siete por ciento de interés

yo voy a dar el seis o el siete por ciento de interés entonces si ustedes vienen aquí a hacer el discurso

todos los demás son muy buenos pero el dinero que se lo quede el muy bueno y que lo pague la banca que queda muy bien pero en fin le tengo que decir que también en las bancas y en los bancos que por cierto no sé por qué no se cita nunca caja laboral aquí también en este tema de

que son inversores y no sé por qué iban a tener que pagar

que invirtieron ahí porque daban unos intereses muy altos y por cierto había overbooking de demanda de esas aportaciones eskerrik asko damborenea jauna

que la prisa es tan mala como consejera como la parálisis hoy toca hablar de carreras carreras sobre quién es más quién llega más lejos

es un lema para el deporte buen lema porque en el deporte siempre hay un final en el espacio o en el tiempo

normalmente la carrera lleva al desafuero a perder pista y a derrapar porque

sé que el señor maneiro a gusto nos quitaría competencias y conciertos

en quitar de un plumazo la capacidad autorganizativa de la fiscalia general del estado aunque en eso como no conozco bien formar parte del modelo federal simétrico cooperativo sabe que la fiscalía ya tiene criterio

egindako kontratuetako baldintza orokorrak baliogabetzekoa ahí tiene lo que piensa el fiscal por cierto algo parecido a lo que pensaba la anterior directora de kontsumobide belén greaves por lo que fue reprobada por este parlamento por la misma regla de tres

repruébele pero es que usted en su carrera como no se ha puesto límites también nos pide que a su vez le pidamos al interventor general del estado

vasco en control y comercialización de aportaciones financieras no he localizado título competencial que lo contemple y lo he mirado en cualquier caso y para cortar el tema yo se lo digo responsabilidad en la cnmv les corresponde toda

y el órgano que dio el visto bueno a los folletos contratos y todos los elementos de la emisión parecería más razonable y resulta su competencia que la propia cnmv analice si las autorizaciones que dio

aquellas se colocaron con incorrectas praxis y como parece que algo hay

y el tiempo nos lo dirá esperemos que en breve eso es lo que podemos pedir que en breve pero es la cnmv a quien corresponde tramitar expedientes si reciben denuncias al respecto

y si detecta irregularidades que las sancione y que obligue al mal comercializador a devolver el dinero mal vendido pueden pedir en su carrera de pedir

en tanto sabe de su responsabilidad en el tema pueden pedirle al gobierno de españa que intervenga en las operaciones de canje con unas condiciones concretas pero saben que tales solicitudes como la del fiscal

aparte de dudosas en su concepción son vacuas son pedir por elevación para seguir pareciendo que se pide más que pedir hay que hacer y eso lo está haciendo el gobierno por mucho que se quiera volver a castigar a quien trabaja

no tengan ninguna duda otra cosa bien diferente es que no haya logrado lo que se quiere usted sabe señora sarasua usted más que otros

que muchas actuaciones incluso las tropelías están sometidas a ser analizadas y sojuzgadas bajo normas y bajo el estado de derecho puede ser un buen momento para

entonces seríamos más dueños de evitarnos problemas

es que en su carrera volver a la carga con la responsable de kontsumobide y con el consejero sabe usted que han actuado con rigor que han trabajado para avanzar pero no usted sigue en su tarea de laminar el trabajo de los miembros del gobierno lo único que le puedo decir es que ese camino no lleva a ningún buen sitio

desde este estrado aprovecho para en nombre del grupo nacionalistas vascos animarles al consejero y a la directora de kontsumobide en su trabajo agradecerle su esfuerzo y deplorar la injusticia

atendiendo a las demandas de quienes al gobierno se han acercado mediando con los emisores y comercializadores para buscar soluciones no las mejores pero soluciones

en cualquier caso las responsabilidades van desde el año dos mil uno en que todos éramos ricos opulentos nos sonreía la economía pasando por todos los siguientes años hasta el dos mil doce en que se siguen comercializando comprando y vendiendo subordinadas hasta que en un paso más de la crisis económica y un sorpresivo cambio de bolsa de compraventa

si a lo largo de este camino desde el dos mil uno hasta el dos mil doce nadie ha demandado ni reclamado operaciones aprobadas y selladas

por cierto un gobierno entre dos mil nueve y dos mil trece en manos del partido socialista

osasun sailburuak eta kontsumobideko zuzendariak en su carrera de pedir

la articulación de canales de ayudas para ejercer su defensa ante la justicia penado mercantil yo simplemente les llevo a la ley

en ningún caso son subvencionables los gastos de procedimientos judiciales

que hacemos los nacionalistas de nuestro estatuto pero

no está exento de cierta lógica miren aquí ha habido una venta de subordinadas que parece que en diez años no provocaron ningún problema el año dos mil doce se destapa la cuasi imposibilidad de recuperar las universidades todos sabemos que unos sabían lo que compraron

no lo sabían a partir de ahí se ha venido trabajando para buscar una solución mientras los jueces iban emitiendo sentencias a favor de los que no sabían lo que habían comprado

pero es una posibilidad más y tal y como dijo el consejero en comisión

ni tampoco ha dicho si es justa o injusta no lo ha dicho simplemente ha mediado para que entidades privadas propusieran un acuerdo de canje no miren al gobierno vasco en este tema

el gobierno vasco ha hecho lo que se le ha pedido sobre si el resultado gusta más o menos podemos discrepar sobre si el canje es mejor o peor

por si alguien tiene dudas nuestro grupo está con los que han perdido su dinero y fueron engañados nuestro grupo impulsa e impulsará todas aquellas medidas que con legalismo y sin carreras

incluso fórmulas igualitarias de canje porque no podemos olvidar que cualquier canje el que fuere no se ajustaría a lo aprobado por ustedes en la moción de junio

se solicitaba la devolución del cien por ciento a quienes no tuvieran perfil inversor

como ven una carrera con contradicciones para ver quién sale más mono y más grande en las fotos de las redes sociales yo por ejemplo

porque como no he abordado el asunto según le parece al gestor de la red social me llaman mamporrero quinqui o gilipollas lo que no deja de ser más que una forma de mala educación pero no entraré en una carrera sin final para bien parecerme y me enfadaré a esos insultos

a la búsqueda de soluciones de quienes fueron engañados ni tampoco pediré ayuda para quienes no lo fueron intentaré ser coherente y apelar al realismo de lo posible sigan su carrera pero tásenla en tiempo y espacio no vayan a agotarse y no vayan a atropellar a nadie y más que pedir a fiscalía o a cmnv por qué no le reprochan sus aprobaciones de subordinadas

o eso no vende y prefieren reprochar al gobierno vasco por apelar muy lejos o muy alto alguien no está más cerca de la solución por apelar muchas veces tampoco

presidenta señor tellería no es ninguna carrera por salir en la foto es la insistencia de varios grupos de esta cámara más bien pocos

todas las iniciativas que sean necesarias para tratar de hacer justicia y solventar esta situación hemos presentado innumerables iniciativas prácticamente de todo tipo y ustedes siempre han dicho que no a todas ellas

siempre han mirado para otro lado siempre lo que se les proponía era un absoluto disparate cualquier cosa que se propusiera era

no había habido estafa no se podía hablar de fraude no se podía hablar de ciudadanos estafados habría que estudiarlo habría que verlo

decir permanentemente que no ha habido una estafa cuando es evidente que sí ha habido una estafa

han sido apoyadas por ustedes ni una sola aunque es cierto que hoy el señor damborenea ya comienza a hablar de un posible delito de enriquecimiento ilícito desde un principio lo que el señor damborenea planteó es que aquí prácticamente no había habido nada y que los ciudadanos lo que habían hecho ha sido no haber leído los folletos que se les entregó

que ustedes han venido haciendo al señor tellería todo le parece injusto menos la emisión y la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas se solidariza con la directora de kontsumobide

y con el propio gobierno pero nunca con los afectados a los que niega su condición de estafados

por la vía de los hechos nunca se solidarizan con los estafados un dedo para solucionar su situación antes está el gobierno después está el partido después está el consejero después está la directora e kontsumobide a esos hay que proteger

a los afectados a los estafados lo justo lo mínimo posible intentar dar largas intentar que se cansen intentar que los grupos parlamentarios bajemos los brazos intentar que a la ciudadanía se les olvide lo que ha ocurrido aquí y evidentemente en esta transaccional que nosotros proponemos

está escrito en el punto número uno de la transaccional todos sabemos de quién estamos hablando de qué estamos hablando dejémonos de reducir este debate

hacer lo que ustedes quieren hacer que es votar en contra de esta transaccional se refiere expresamente

a eroski y fagor instar a la fiscalía general del estado y a la fiscalía del país vasco es algo vacuo la alternativa suya es cero no hacer nada no mover un dedo

nosotros seguiremos y volveremos a instar o instaremos a la fiscalía para que se involucre en este asunto se trata efectivamente de cumplir las leyes sabemos lo que dice la ley de creación de kontsumobide en relación a sus funciones en los puntos d

y colaborar activa y económicamente con ellas impulsar la protección legal efectiva de las personas consumidoras y usuarias iniciando las acciones judiciales pertinentes

por lo tanto entendemos que aquí tampoco se ha cumplido la ley pero es que además de no cumplirse la ley el gobierno

las directoras de kontsumobide no han estado a la altura el partido nacionalista vasco no ha estado a la altura

no han estado en absoluto a la altura esta es la realidad de los hechos

ha hecho lo menos posible intentando que la estafa se olvide que los afectados se cansen y que los grupos parlamentarios no hagamos

no se trata de exprimir hasta el límite sus competencias señor tellería sino de que cumpla la ley de que se ponga del lado de los ciudadanos estafados del lado

ha terminado avalando un acuerdo inaceptable e injusto y por lo tanto ha terminado en nuestra opinión avalando de este modo

o no pero nosotros también podemos decir que nos parece claramente injusto y podemos rechazarlo y podemos venir a este parlamento a decirlo

es injusta y a seguir defendiendo los intereses de los afectados se ha hablado aquí de responsables señor damborenea

los responsables en nuestra opinión son claros son las entidades emisoras fagor y eroski que son los que tienen el dinero efectivamente

y también son los responsables las entidades comercializadoras que

fraudulenta colocaron estos productos que es un producto tóxico a miles de ciudadanos y este parlamento también es responsable no solamente cuando se niega a votar este tipo de transaccionales o este tipo de propuestas sino cuando en el año dos mil modificó la ley de cooperativas maneiro jauna amaitzen joan también es responsable y

también es responsable y el gobierno vasco y kontsumobide y en general todos aquellos que miran para otro lado aportar en lugar de restar que es lo que ustedes han venido haciendo todo lo que se proponía a ustedes les parecía mal también esto nosotros en todo caso seguiremos insistiendo

cada viernes en las puertas de este parlamento llueva o nieve

y también en otras provincias también meten ruido por lo tanto eso es interesante dice eh bildu que su propuesta es la única que soluciona el problema

ha leído su propuesta léela por favor yo no voy

y sobre todo le tengo que recordar y de verdad que no estoy desmemoriada de momento que el punto cinco de aquella transaccional del seis de junio no salió porque ustedes votaron en contra de hecho luego el partido socialista metió aquí una proposición de ley donde modificábamos la ley de cooperativas precisamente en esa cuestión que por cierto que tampoco salió adelante

entiendo que ese debate vendrá a este parlamento seguramente que por ahí algún punto de encuentro tendremos partido popular señor damborenea

usted está sorprendido por lo que nosotros décimos pues yo como portavoz socialista no estoy sorprendida por lo que usted dice que no se habla de fagor y eroski señor damborenea pues no ha leído ni el título porque

con el título ya das pie a los puntos y además en los puntos también aparece nadie de los que estamos aquí dice usted podemos decir que afecten o no afecten a los afectados

ya lo hemos dicho en mi anterior intervención he dicho yo que somos respetuosos con lo que decidan las personas afectadas pero

nosotros no con la actuación de este gobierno no con la actuación de la dirección de kontsumobide no con la actuación del propio consejero creo que hay una ley fundacional de kontsumobide

y hay un código ético y estará para respetarlo porque ahora qué va a ser que las leyes son para no respetarlas o según le venga bien a unos o a otros

que a los afectados les corresponde la justicia gratuita señor damborenea usted no sabe que cuando una persona

y no puede ser ni perceptor de la renta de garantía de ingresos eso es así

que hay que pagar y hay que pagar tasas abogado procurador efectivamente pero lo que usted se olvida de decir es que si

y obtienen la razón como está siendo esas tasas las paga las entidades financieras en este caso

emisoras y al partido nacionalista vasco al señor tellería en principio le quiero decir que en algo estoy de acuerdo con usted yo repruebo en nombre de mi grupo

insultante que se dé en cualquier entorno incluso en las redes sociales y desde luego que por ahí vaya la solidaridad de mi grupo para con esa cuestión por lo tanto quiero dejar claro

que el grupo socialista no castiga a su gobierno como ha dicho usted castiga a quien trabaja lo ha hecho así de manera como lo dice usted aquí

entonces yo le digo a usted que nosotros entendemos que las cosas hay que hacerlas de manera diferente a como se están haciendo porque kontsumobide es un buen instituto muchos trabajadores muy eficientes y nosotros entendemos que la forma en que este gobierno está dirigiendo kontsumobide no es la correcta porque vulnera la propia ley fundacional

de su gobierno ustedes dicen que hay que actuar con rigor pues mire con rigor estamos pidiendo que actúen y pregúnteselo también a las personas afectadas porque nosotros no es que pedimos responsabilidades nosotros lo que queremos es que se defienda a los consumidores

legitimado y le quiero decir también que en el congreso el partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados en madrid decía que había una estafa generalizada al referirse a las preferentes

a los afectados eso lo decían ustedes en el congreso pero yo no sé debe ser que las preferentes españolas son distintas a las subordinadas vascas la diferencia es que hay tres partes pero el fondo de la cuestión es la misma hay personas afectadas que se sientes engañadas entonces pues bueno y yo usted

los sabios no tienen prejuicios ni preferencias los sabios se ponen siempre del lado de lo correcto nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua

existía un consenso por lo menos en algo que es que este gobierno no estaba haciendo en relación a las subordinadas y en relación a solucionar el problema de

desde este parlamento a través de varias mociones el problema es que cuando seguimos en esta línea y se nos habla y sobre todo parece que se nos cita

para el ruido de la calle se nos olvida que cuando estamos intentando debatir aquí estamos intentando proponer soluciones lo que no estamos trayendo son más aristas a un problema que ya tiene suficientes y sobre todo porque ustedes tampoco dicen la verdad es decir ustedes dicen que vayan a la fiscalía que la fiscalía actúe

a eroski y fagor con lo cual el problema seguiría estando porque son productos legales más que nada no le digo porque

y entonces los y las afectadas seguirían teniendo el mismo problema y mientras tanto mientras ese camino se recorrería seguramente la imaginación de algunos de ustedes nos seguirían trayendo muchas más posibilidades a la hora de mantener este problema

desde euskal herria bildu creemos que el día seis de junio se dieron soluciones se dieron bastante claras se matizaron además

y sin tener que seguir aumentando el índice de implicados en dicha resolución y sobre todo atendiendo a otros entes

que no solo no dan ningún tipo de confianza sino que seguramente y no seguramente sino que han sido parte de ese problema y de esa estafa cuando

bien recibidos en la modificación de la ley de cooperativas

le invito a que se lea ese acta pero para que vea

y tenga que venir aquí a retractarse de lo que ha dicho le voy a explicar euskal herria bildu defendió en aquel momento la necesidad de traer la ley

y también del modelo de financiación de las cooperativas y lo dejamos claro en la primera vez lo dejamos muy claro en esa ley desde euskal herria bildu no íbamos a contemplar

como posible la existencia de los productos subordinados con lo cual no somos bienvenidos

estábamos desde el principio y usted lo podrá leer y tendrá que venir aquí también a retractarse porque nosotros no solo queremos hablar

que nos parece un punto igual más interesante incluso que ese modelo de financiación decía el señor damborenea señor

o mal sobre los bancos que todo lo que pueda ser el problema de los y las afectadas decía usted

hablaba de enriquecimiento ilícito que va contra la ley que lo hable para defender a los bancos por lo menos

hablaba de que si creíamos desde euskal herria bildu que es un producto de alto riesgo por la

subordinados son productos de alto riesgo y así están catalogados como productos de alto riesgo y que un producto financiero tenga alto riesgo

la consecuencia de ello son los intereses eso es así siempre ha sido así evidentemente los altos intereses si no se dice claramente

se van a pagar porque son productos de alto riesgo o productos complejos financieros

se está omitiendo esa información que es la omisión que muchos de los y las afectadas echan en cara en este caso a las comercializadoras

evidentemente y creo que ha sido bastante desafortunado que el señor tellería haya utilizado también su intervención para defender la reprobación

el trabajo de kontsumobide es el que es las funciones son las que son y esa persona lo que se dedicó

de personalidad y de autobombo fue a defender a quienes no tenía que defender en este caso a la parte más fuerte en este caso a eroski fagor y a las entidades comercializadoras

porque en este momento tenían miedo de perder sus ahorros mientras que durante toda su participación con esos productos financieras había disfrutado de grandes intereses el problema no está ahí el problema está que en esa comercialización se realizó un fraude que ese fraude fue realizado por las entidades financieras y que la solución parte centrar ese debate en las entidades financieras no trasladarlo a otros o no añadir más aristas a este debate como quiere el señor damborenea que no aportan nada y que a los

también para bildu yo no he dicho delito de

enriquece injustamente a costa de otro evidentemente hay que devolverlo y no es delito

en su momento y décimos lo mismo que dijimos en momento

estaban haciendo ustedes a determinadas empresas y flaco favor les hacía el gobierno vasco con una

desde kontsumobide o como lo quiera usted llamar lo dijimos antes y lo décimos ahora exactamente igual que lo decíamos antes y lo décimos ahora

desde el principio y nosotros nunca hemos dicho que es una estafa ahora resulta que la panacea de este asunto es que modificar la ley para que las cooperativas

y por qué no van a poder utilizarlo oiga si quieren lo quitamos pues que compitan con el resto de empresas en desventaja por qué no van a poder utilizarlos si se utiliza bien

porque aquí nadie se ha quejado de los intereses que están cobrando aquí lo que se han quejado

deuda perpetua no se han quejado de que sea subordinada que es que es el último crédito en la prelación cuando hay una suspensión de pagos no

perpetua no se ha quejado nadie nadie ha alegado si era subordinado

pues vamos a ver de qué estamos hablando de que las cooperativas no tengan que

competirán en desventaja con otras empresas solucionamos algo nada pero bueno

por eso se pagan esos tipos de interés y no el uno como se estaba pagando por otros productos en la misma época claro

y por qué es de riesgo alto más o menos porque como es perpetua nunca se sabe

nunca se sabe o a lo mejor resulta que los tipos de interés suben tanto que el siete por ciento se queda muy bajito

tanto negocio y evidentemente dependiendo de la solvencia del que emite esas obligaciones sean perpetuas o no sean perpetuas y cuando se dice que el canje que se propone es de muy alto riesgo

en fin no es muy recomendable para invertir en ella y cuando se está viniendo aquí a decir que no hay nos oponemos y nos parece muy mal que la empresa refinancie su deuda de una forma o de otra

y evidentemente no tengo duda de que los inversores saben de qué es lo que se les está planteando y desde luego en su momento es posible que engañaran a uno o a muchos

hoy a pocos no creo que hoy necesiten tantos valedores para explicarles los riesgos

y evidentemente nosotros votaremos a favor de los puntos en los que estamos de acuerdo

y en otros no pero ya se lo he dicho señor maneiro y al partido socialista

por elevación a más cosas y tal en realidad hoy a qué veníamos a quejarnos de la gestión de kontsumobide

o a qué se venía o se venía a solucionar algo de los inversores en este momento y en este momento ya solo podemos hablar

porque las de fagor suspensión de pagos el juez decidirá

ya han vencido esas ya no son perpetuas ya han vencido

como le digo pues en su momento dijimos que algunos de ustedes estaban haciendo un flaco favor a empresas muy importantes de este país que tienen muchos puestos de trabajo y que peor lo estaba haciendo el gobierno vasco

y no dando soluciones reales a la gente que sí tenía que haber tenido esas soluciones reales de parte de kontsumobide que no son todos los que invirtieron

y usted dijo y se dijo que esa propuesta no citaba a eroski y fagor

como la que ustedes han presentado hoy parece que la cosa va evolucionando es decir nadie tiene razones

de las subordinadas independientemente de la caída de fagor sí aparece fagor y eroski aparecen al principio de todo pero no como responsables ya ustedes responsabilizan todo a los bancos que es lo que nos reprocharon a los demás

determinante de una más difícil solución para los compradores de los bonos

a parte de la mediación que ha aportado una solución intermedia y universal las sentencias

unas responsabilidades por la mala praxis y se les está sentenciando a devolver el dinero independientemente

extraños o friquis que se estén produciendo en la medida en la medida que los bancos van a recurrir el tiempo se alarga y el coste de todo esto se incrementa en esa situación y también

entre las partes y ha propuesto algo que insisto no lo ha hecho suyo ha buscado una solución que le han propuesto entidades privadas que insisto gustará más o menos pero es una posibilidad más que los ciudadanos tienen no se la nieguen no se la nieguen es una posibilidad más porque imagínese que viene el consejero y la directora de kontsumobide el otro día al parlamento y dicen

la que estaríamos montando hoy aquí la que estaríamos montando hoy aquí porque no se había encontrado ninguna posibilidad y por cierto

aténgase al lenguaje jurídico aquí no hay estafa ninguna sentencia ha hablado de estafa ninguna ninguna y la estafa es un concepto jurídico es que además siempre han querido sacar a kontsumobide del asunto

siempre han estado a favor de sacarlo eso sí que ponga todo el dinero que les dé cosas no puede ser no puede seguir este modelo no puede seguir y ya lo de llevar a la comisión de ética por haber faltado cuando la directora insistió en aquella comisión en que todo era

por cierto lo mismo que un periódico de larga tirada dijo y usted ha dicho hoy señora sarasua que

no obliga a pagar costas a los afectados se sometería usted

porque no es verdad les obligan a pagar las costas por qué muy sencillo porque solicitaron tres demandas

en una en un tema y en otros dos les desestima la nulidad de condiciones generales de contratación

las costas de esta reclamación son impuestas a los actores

no diga medias verdades diga la verdad por cierto

no había apelado yo a eso le agradezco la solidaridad sobre todo

que es la mejor manera de ser cobarde muchas gracias eskerrik asko tellería jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

para pedir la votación por puntos de la enmienda transaccional si puede ser

bai quería agrupar los puntos tres seis barkatu los puntos tres seis y siete tres seis

y así supongo que con la pompa y el beato que lógica y necesariamente acompaña estos actos entre genuflexiones

se piensa celebrar en bilbao la llamada cumbre españa de la estabilidad al crecimiento y no les negaré que a nuestro grupo le provoca cierto desazón pensar siquiera en el distanciamiento con la realidad desde nuestro punto de vista rayano lo psicopático que pueda tener aquel que frente a la crueldad de la situación que vivimos cada día más y más personas

a modo de envoltorio para la mayor concentración de responsables directos del empobrecimiento colectivo devaluación democrática y vulneración de derechos sociales y laborales que jamás se hayan dado cita y congregado en euskal herria son justo aquellos que quieren elevar la cleptomanía y el expolio de lo público a categoría de arte

y los derechos sociales y laborales de la ciudadanía en una especie en vías de extinción dicha concentración de alta peligrosidad

que ni a euskal herria ni a bilbao ni a sus gobiernos los puedan relacionar de forma alguna con ello y para eso no hay mejor forma que no acudir no participar de ese festín o mascarada por las fechas en las que se va a celebrar que parece sacado realmente del medievo ya que a tanto noble y servil vasallo enfrentado también a un pueblo esclavo

ya ha confirmado su asistencia y donde mejor que entre sus conmilitones para seguir recuperando ritmo de crucero y es que esa cumbre según sus organizadores

es un punto de encuentro y debate entre personalidades evidentemente se refieren a ellos mismos como personalidades nosotros tenemos otro concepto

lo definen como un punto de encuentro y debate entre personalidades de primer nivel internacional en el ámbito de la política la empresa instituciones y organismos internacionales con responsabilidad

en las políticas públicas por tanto no somos nosotros y nosotras no es eh bildu ni todos los sindicatos de este país

ni siquiera los más de doscientos profesores de economía de la universidad del país vasco y de la universidad de deusto quienes le hacemos responsables directos de nuestra precarización o nuestro empobrecimiento

los que se señalan como responsables de las políticas públicas los que se señalan como responsables directas como digo de la precarización a la que están enviando al conjunto de la ciudadanía de la pérdida de derechos laborales y sociales de la falta de transparencia en sus decisiones

son ellos mismos quienes asumen su responsabilidad o se jactan de ella en las políticas públicas

que escucháramos otras posiciones y como ningún consejo debe caer en saco roto lo hemos echo y nos hemos encontrado por ejemplo con una posición que nos parece interesante

y como comprenderán ustedes no parece que todavía hayan adoptado una vertiente revolucionaria ni tampoco un amor

hacia los paraísos latinoamericanos no parece que ese sea el caso y sin embargo dicen lo siguiente que ese foro nace viciado y hay que recordar a los participantes que las políticas económicas vigentes

pobreza exclusión social y recortes en derechos sociales para millónes de personas eso lo dice cáritas lo dice la iglesia vizcaína con la que evidentemente

y lo dice porque quienes van a participar en esa cumbre se señalan como responsables directos ellos en la definición que han hecho del foro lo han señalado así su responsabilidad en las políticas públicas y ante eso qué hace este gobierno acudir cierto es que en los últimos días parece que está intentando enfriar el entusiasmo

y muy diversos entre sí que provoca este foro y así

pasa y a ver si se va y eso lo decía en una radio pública hace escaso días

bitartean lana duintasuna etorkizuna bizitza se puede y se les debe poner freno y se puede hacer ya pero mientras llega ese momento

digámosles por tanto un no rotundo porque tenemos ya el lugar como se señalaba en una intervención anterior sobre otro punto

y el tiempo es un tiempo marcado por la crueldad de las consecuencias que está acarreando sus políticas económicas las políticas económicas que preservan a aquellos que están expoliando

de los ciudadanos y ciudadanas para mantener su estatus para mantener sus privilegios ellos no entienden probablemente que la economía ha de estar al servicio de las personas y no las personas al servicio y al blindaje de sus intereses económicos y con esto no les estoy hablando tampoco de la revolución bolchevique que por cierto tenía una máxima bastante sencilla que probablemente incluso en esta cámara asumiríamos del todo aquella de pan tierra y trabajo pero como digo no les estoy hablando de esa realidad les estoy hablando de algo muy sencillo que podría ponernos a construir en una dirección diferente de la que plantean quienes se van a reunir en esa cita en bilbao en el guggenheim en ese palacio que les hemos construido

a la medida de parece sus necesidades mientras los demás estamos fuera y a poder ser enfrente para que nos oigan pero como digo

una realidad diferente y una realidad diferente que se basa no sé si en el sentido común pero por lo menos en el respeto a la dignidad de las personas porque se podría hablar de igualdad o de equidad

el intenso y doloroso incremento de la desigualdad producido en los últimos años

presentes en las constituciones de dichos estados y en las declaraciones de principios de la propia unión europea

a la segunda guerra mundial la creciente desigualdad y la expulsión de la vida social de un número de personas cada vez mayor además de ser incompatibles con los valores democráticos

humanistas se podría hablar de la competitividad y se podría decir que la competitividad no debe ser presentada como un fin en sí mismo sobre los que organizar la vida económica en su conjunto que la eficiencia social es decir el bienestar de las personas y la eficiencia ecológica

han de anteponerse y han de dar sentido en todo caso a esa lectura de la competitividad

no puede haber una economía sana y viable que no es posible una economía justa y eficiente basada en la opacidad y en la imposición

ni desde la ocultación de negocios al control y el escrutinio público que no es posible seguir manteniendo unos objetivos basados

no podemos seguir escudándonos en la complejidad de las cosas para dotarlas de una aureola técnica que les sitúa fuera del alcance de las personas

en una cuestión restringida a expertos la vida económica no puede establecerse contra la opinión de las mayorías o sobre la resignación de las personas que desean otras opciones

y podríamos hablar también de las finanzas públicas y decirles que las finanzas públicas no son el origen de la crisis y su equilibrio debe tratarse con cautela que dicho equilibrio debe plantearse además como un objetivo indisoluble de la lucha contra la corrupción la evasión fiscal y el crecimiento de los mercados financieros ocultos y fuera de control que en una situación de emergencia social como la que nos encontramos el equilibrio de las finanzas públicas no solo debe evitar el gasto

de los provenientes de quienes se encuentran en mejor posición económica de cara a mantener los servicios públicos esenciales capaces de garantizar la equidad y la justicia social y podríamos hablarles también de la crisis social de que esta crisis social es ante todo y sobre todo una crisis de convivencia dentro de la lógica sistémica de crisis en la que subyace

que puede ser además compatible con una mayor conflictividad social sino que se necesita un crecimiento orientado a la creación de empleo digno de valor social y de oportunidades para todas las personas

por ello es fundamental y se considera necesario otro enfoque que ponga a las personas en el centro y que sitúe a los mercados y a las instituciones al servicio de la sociedad y no al revés la crisis no podrá darse por superada hasta que haya sido resarcido el daño causado por la misma en la cohesión social todo esto que he leído no es el programa electoral de eh bildu

todas esas personas que no tienen alternativa toda esa gente que protestamos por el no por el no que ha sido capaz de concitar el consenso de más de doscientos profesores universitarios de la universidad del país vasco es muy posible que no escuchen a euskal herria bildu que vuelvan a señalar que nos movemos en el discurso del no por el no de la confrontación que nos faltan alternativas

salvo que entiendan que todos estos profesores también obedecen a una lógica de penetración de bildu en la universidad para adoctrinar a futuros ciudadanos y ciudadanas como algunos se atreven a decir en nafarroa como supongo que esa no es la lectura y creo

tengan en cuenta la opinión de esta gente tengan en cuenta la opinión de las más de quinientos firmas recabadas

los entresijos de la realidad económica tanto global como nacional y también de la que se pueda dar en lo local y a partir de ahí desde luego encontramos un manual de acción política muy claro que nos confronta directamente con los señores de la troika que van a venir a pasear sus

sus ideas en bilbao y nos parece además que eso es como les decía un insulto y un escarnio a las decenas de miles de personas que en este país lo están pasando realmente mal y nos parece que brindarse como gobierno a participar de esa mascarada porque se participa de esa mascarada como agente o como persona invitada ni siquiera con perfil protagonista no es ponerse

no es como se decía antes cuando se hablaba de la igualdad social y de la equidad ponerse del lado de las personas sino que es situarse del lado de quienes están arruinando la vida de las personas

presidenta por lo que le he podido entender señor matute entendemos que ustedes no quieren que el lehendakari asista a la cumbre me ha parecido entenderle que es lo que usted proponía y evidentemente es una petición

respetable pedir al lehendakari que no asista a esa cumbre de hecho ustedes piden que no que renuncie a participar en esa cumbre no les gusta el título no les gustan los participantes y piden también que en fin suspenda

que no asistan y que apoyen las movilizaciones digamos que es una opción entre otras muchas y yo creo que aquí básicamente hay dos preguntas

debe estar presente en esa cumbre nosotros pensamos que sí incluso para decirles que no a las políticas que se van a defender allí o algunas de las políticas que algunos de los allí presentes van a defender o han venido aplicando durante los últimos años pero pensamos que sí que el lehendakari debería estar y que el lehendakari no debería de hecho desaprovechar esa oportunidad

en esa ocasión el programa político de upyd pues sería ciertamente extraordinario

evidentemente pero en todo caso nosotros con nuestra enmienda sí que le hemos propuesto qué es en nuestra opinión lo que debería defender

de tal forma que digamos no desaproveche esa oportunidad por lo tanto debe estar o no debe estar el lehendakari en esa cumbre en nuestra opinión sí y si está para qué pues en nuestra opinión y hay varias enmiendas

una serie de cuestiones que consideramos básicas y que están perfectamente recogidas en nuestra enmienda digamos que la enmienda del partido nacionalista vasco le propone otra cosa

una serie de iniciativas y nosotros lo que le décimos al lehendakari es que defienda una política económica

una política económica que tenga como objetivos prioritarios el fortalecimiento del estado del bienestar la atención a los ciudadanos más afectados por la crisis económica

y las inversiones productivas el impulso de la innovación el emprendimiento y la internacionalización de nuestras empresas una política económica basada en las personas

en euskadi una fiscalidad justa y progresiva la lucha permanente contra el fraude fiscal la modernización del entramado institucional y la racionalización del sector público societario de modo que los recursos públicos se destinen a satisfacer las necesidades de los ciudadanos etcétera a nosotros nos gustaría que el lehendakari no desaprovechara esa oportunidad y dijera todo esto

defienda políticas económicas y sociales justas que tengan en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos y es lo que nosotros le pedimos en esa enmienda

si me invitaran a mí es lo que yo haría y creo que lo que haría cualquier representante responsable estar

esas cuestiones pero no desaprovecharía esa oportunidad para defender aquellas ideas en las que en este caso

enmienda que aproveche esa oportunidad que se oponga a los recortes sociales a las políticas de exclusión social a las políticas que han incrementado las desigualdades

la reducción del déficit a cualquier otra cuestión y que aproveche ya digo para reivindicar otro tipo de políticas creo que para eso debería estar el señor lehendakari lo mismo que el señor matute desde esta tribuna ha defendido cuáles son sus propuestas

está bien que baje aquí a la tribuna a defender esas propuestas pues nosotros

para defender nuestras propuestas o aquellas propuestas que nosotros consideramos justas y en ese sentido

por el grupo socialista a diferencia por la enmienda planteada por el partido nacionalista vasco

condescendiente pues la enmienda del grupo socialita

y ahí están planteadas se podrían plantear otras etcétera pero en fin creo que lo que se propone ahí pues también es defendible

a apoyarla imagínese por un momento que el lehendakari asiste a esa cumbre

dice algunas de las cosas que nosotros planteamos en nuestra enmienda o incluso alguna de las cosas

pues estaría muy bien tendría repercusión y creo que estaría muy bien y creo que es lo que usted debería hacer

presidenta señorías no estamos de acuerdo con

presenta bildu por eso hemos hecho una enmienda aunque sí estamos de acuerdo

que en vísperas de que se celebre esta cumbre se haga un debate en el parlamento y que el parlamento se posicione y al igual que ha dicho el portavoz de upyd

acuda a esa cita y con que el lehendakari además de ser en cierto modo anfitrión por albergar esta cumbre en el país vasco también tenga

que en esa cumbre van a ser tratadas y que en función de cómo se traten pueden ser importantes para los objetivos económicos y sociales del país vasco

el país vasco nosotros en estos momentos compartimos en este país un acuerdo para la sostenibilidad para la modernización el impulso económico compartimos una política presupuestaria y compartimos una política en la que se trata de hacer un esfuerzo

de defensa de servicios públicos de defensa de políticas sociales de impulso de la inversión pública de creación de empleo en fin de tantas cosas que hemos venido hablando aquí y yo creo que esa es la posición que de alguna forma resumida en nuestra

respetando la autonomía del lehendakari respetando su capacidad para como lehendakari expresar aquello que crea oportuno yo creo que esto es lo que también debiera de representar

entre otras cosas porque son compromisos de este parlamento son compromisos de su gobierno son compromisos que hemos ido adquiriendo en los debates que hemos hecho en esta cámara

en el pleno de fiscalidad bien sea en el pleno de política de empleo en muchos momentos en los que hemos hecho debates expresos sobre determinadas políticas por lo tanto a nosotros nos parece muy bien que el país vasco no esté mudo quizás he exagerado

en esa cumbre no esté solo de forma protocolaria sino que esté también con contenidos

en esa cumbre que si no hay un cambio de política económica fiscal

en el marco de la unión europea va a ser muy complicado que sin relajación del déficit sin dinero puesto

cuando llega a quién lo necesita lo llega a unos costes que son inasumibles sin una política de estimulación de la inversión pública sin una política donde

entera se comprometa con la creación de empleo desde la inversión pública además de estimular la de la inversión privada esto es imposible de hacer y usted va a estar va a tener la oportunidad de estar reunido con la presidenta del fondo monetario internacional con

con bancos de otros lugares del mundo de otros continentes con las principales empresas españolas

al mundo de la inversión de la exportación de la internacionalización de las finanzas y

que nos debe de unir y nos debe de poner en común a todos los que queremos salir de esta crisis y que además podemos tener denominadores comunes para salir de ella

desde la oposición una política de máxima responsabilidad comprometida con la ciudadanía vasca para ayudar a salir de esa crisis en acuerdo con el propio

y muchas veces en acuerdos puntuales con otros grupos políticos también de esta cámara

yo creo que es también poner una hoja de ruta ante que tiene una mirada distinta a la nuestra que lo social le preocupa menos y que solamente se preocupan algo de lo social

movimientos de carácter especulativo y en sus objetivos económicos solamente para que quienes más tienen sigan acumulando muchos más recursos por lo tanto yo creo que aquí que hay una política que está

y que da unos resultados porque también tenemos unos indicadores unos indicadores en el empleo

unos indicadores en la economía que son mejores que en otros lugares porque hay una política que tiene diferencias significativas con las que se hace en otros lugares yo creo que esto hay que ponerlo en valor la hoja de ruta la senda el camino por el que hay que trabajar creo que aquí lo hemos definido y por lo tanto esa definición que está en práctica que es posible que se pueda hacer otra fiscalidad que se pueda hacer otro esfuerzo que se puede sostener lo público y lo social que es necesario sostenerlo pero que además se puede esto hay que contárselo a los que están permanentemente con sus políticas económicas internacionales tratando de reducir

de reducir todo lo social y de convertir los aspectos públicos y sociales más interesantes y más rentables simplemente en un negocio privado por lo tanto yo creo que

esta cumbre no debe de pasar inadvertida en el sentido que lo estoy planteando esta cumbre es un momento extraordinario e importante

para dejar nuestra posición política una posición política que está avalada como he dicho por actos firmes de este parlamento

usted quiera recoger algunas de estas ideas algunas de estas sugerencias y trasladarlas

es en la que hemos presentado la enmienda por lo que he visto hasta la fecha creo que esto va de que no salga nada porque nadie ha hecho un acercamiento con nadie pero

el testimonio de cada cual quedará aquí y el nuestro es este eskerrik asko prieto jauna

ez duzu jarraitu irakurtzen besteak beste no hay una única forma de hacer las cosas

y que pueden plantearse propuestas alternativas con sólidos fundamentos

no hay forma de plantear propuestas si uno no va donde puede

jarraitzen du testu honek en cuanto a la unión europea consideramos que está en condiciones de plantear un camino diferente de eso se trata y eso también hay que proponerlo en el lugar donde a uno le inviten y le den la oportunidad de poder expresarse y plantear

valor a este documento usted habla de doscientos profesores y profesoras

de las universidades vascas de la upv y de la universidad de deusto ha dicho

está también la de navarra pero quiero decirle que hay muchísimas universidades que no son las vascas universidad de olavide instituto politécnico de oporto complutense de madrid universidad rey juan carlos

y también entre las quinientos firmas si usted ha leído efectivamente con detenimiento el documento

constriñen condicionan la calidad de las decisiones adoptadas condicionan las conclusiones extraídas

me da la sensación de que están llenos de prejuicios de que están llenos de prejuicios que les impiden ver más allá de sus propias suposiciones que les impiden avanzar más allá

escuchemos nada que merezca la pena pero desde luego hay que aprovechar la oportunidad de escuchar a quien nos invita a escucharle como han invitado

no hay que rechazar la opinión de nadie porque no sea de nuestro agrado ni en este ni en ningún otro ámbito desde nuestro grupo parlamentario defendemos una posición abierta hacia todas y todos con humildad y con vocación de aprender eta partekatzea

necesitamos oportunidades para avanzar y también en este foro pueden hacer oportunidades de interés para nuestras empresas ez dugu aukera bakar bat galduko

baina inon ez dago zehaztuta nosotros defendemos trabajar desde dentro no agarrando la pancarta en la calle a la espera de lo que pueda pasar

eta hau da gure eredua y no debemos perder

en el próximo foro de economía porque señor matute solo quisiera preguntarle una cosa pueden ustedes definir su propio modelo sin insultar al de enfrente y desde el respeto lehendakari